es que se ha pagado la multa hemos pagado la multa entre todos y todas y los responsables políticos de esta multa siguen en sus trece sin admitir el error sin admitir que intentaron chulear a las autoridades europeas siguen manteniendo

lo que debían y lo que es aún peor se permiten repartir culpas entre los demás y dar lecciones de rectitud

un error fruto de la irresponsabilidad un ejemplo de altanería hemos escuchado todo tipo de excusas razonamientos forzados reparto de culpas a terceros por parte de quienes han estado en todo momento justificando lo que hicieron pero ha sido del todo imposible escuchar

berriro dakarzu hona eztabaida zikintzeko asmo hutsarekin porque usted representa a un partido político que ante la incapacidad de plantear iniciativas positivas constructivas que redunden en mejora de la calidad de vida de las personas se dedica a ejercer la política acusación pretendiendo sacar rédito del hartazgo de la gente con las y los políticos

cuya agenda política está fijada por algunos medios de comunicación que explotan el sensacionalismo político como línea de negocio quieren lograr ustedes por otros medios lo que son incapaces de lograr en las urnas no obstante a pesar de sus esfuerzos por desprestigiar

sabe discernir y usted representa a un partido político

mientras que los veintisiete parlamentarios y parlamentarias que estamos aquí representamos

hemos hecho algunas cosas mal otras regular y otras bien muy bien sabe discernir y ver la diferencia entre unas actuaciones y otras por mucho que usted pretenda meter todo junto en la misma bolsa de la ropa sucia díganos una cosa

upyd a la sociedad vasca además de crispación ondo egingo lukete judizializazioaren bideari

jauna arraiz asegura que ha llegado el momento de alejar los debates políticos de los juzgados que los juzgados no son el sitio para este tipo de debates

ez dira epaitegiak sin embargo curiosamente bildu olvidando las declaraciones

va de la mano de upyd en la estrategia de judicializar la política vasca cuando a ustedes no les afecta porque hoy en la enmienda de bildu tenemos ejemplo de ello el tercer párrafo señorías de bildu es copia exacta copia literal del tercer párrafo de upyd los dos primeros párrafos los votaron el tercero era el que era diferente sin embargo ustedes lo copian no sé ni por qué

no sé ni por qué han presentado porque hoy tanto si desgraciadamente la propuesta de upyd saliera como si saliera la de bildu la que sale es la de upyd ustedes creen que la sociedad

dónde está el límite si por la acción irresponsable de algunos partidos políticos se diluye la diferenciación clara entre los ámbitos político y judicial con intencionadas interferencias entre ambos el riesgo de judicializar la política es evidente la de su inversa que es más preocupante el riesgo de politizar la justicia bilduri proposamen bat luzatu nahi diogu benetan

una vez más porque creo que es la primera vez que veo que alguien trae a este parlamento para que volvamos a votar lo que ya se votó y se le aprobó con lo cual no sé si está buscando a ver si a la segunda o a la tercera la pierde o sea no termino de entender porque

este tema lo vimos exactamente este tema es que usted ha fusilado los dos primeros puntos de lo que se votó en este parlamento a finales de mayo pasado y nos lo vuelve a traer a votar no puedo entender que cuando un grupo en un periodo de sesiones lo que plantea no se aprueba

cuando se le aprueba me cuesta encontrar cuál es la novedad

calcados hasta con las comas es decir poco o nada hay que discutir

resulta que tampoco es novedad porque lo que dice es y pedimos que el parlamento vasco inste a la fiscalía y dice no la fiscalía ya está

los dos primeros puntos ya se aprobaron la fiscalía ya está estudiando el asunto

hoy aquí a qué hemos venido y entonces queda el otro punto es que a los que se censuró desde este parlamento no han hecho autocrítica

pero señor maneiro eso es un tema que en fin qué quiere que le diga

ya le dije nosotros en quien fijábamos la responsabilidades y la mala gestión de lo que había pasado evidentemente y hay otra cosa que yo al partido nacionalista vasco hoy no se lo puedo volver a dejar pasar es decir

es verdad que la unión europea se cargara las vacaciones fiscales porque no nos consideraban un estado porque no teníamos competencias suficientes no es verdad se nos aplicó la misma normativa que a todos los estados miembros lo que pasa es que las diputaciones no hicieron una cosa que se exige a todos los estados miembros incluso cuando se fusila

que es que hay que comunicarlo a la comisión y a lo mejor

se les olvidó entre comillas comunicar a la comisión que se aprobaba esa normativa que era específica y distinta al del resto del territorio

se anularon porque hubo una empresa vasca llamada grupo mondragón que lo denunció a bruselas y qué denunció eso entonces no es que el concierto económico tenga un tratamiento no no se gestionó mal y yo dije y no voy a repetir el discurso de hace cuatro meses y lo que nosotros opinábamos y por qué nosotros no apoyamos esa normativa porque no nos parecía adecuada y además

en muchos casos y lo dije fraudulentamente y el lío con las comunidades autónomas vecinas vino del uso fraudulento que se hizo sobre todo en álava de ese sistema

y a partir de ahí tuvimos líos con europa y líos con las comunidades vecinas y líos con todo el mundo porque el concierto económico estaba

y un abuso del concierto económico y la sanción

todo el mundo sabemos por qué fue la sanción y todo el mundo y no lo voy a repetir el debate del otro día

pero visto lo visto dentro de cinco meses lo volveremos a tener porque si ya da igual que se apruebe o que no se apruebe en esta cámara para que los grupos volvamos a traer lo que ya hemos debatido hemos votado e incluso se ha aprobado pues a partir de aquí

me extraña sobremanera

el primer punto que era instar a que se paguen inmediatamente la multa ya lo han hecho las instituciones vascas

repita lo que se exigía a finales de mayo cuando ya está cumplido y hecho está cumplido y hecho y además en la forma en la que los grupos

casi por unanimidad en esta cámara en ese debate se dijo que estaban de acuerdo en hacerlo

a usted le gustaría que hicieran autocrítica algunos responsables del pnv sí bien a mí también

usted me puede decir que me puede plantear lo que quiera pero qué votamos

ver si a lo mejor lo que se aprobó a finales de mayo

y es que no se pague la multa que ya está pagada a lo mejor porque falte un parlamentario o dos o porque alguien cambie el sentido de su voto

yo con perdón nos parece todo poco serio y lo que sí queremos recordar es que los paganos de todo esto de esta mala gestión de este mal uso del concierto

fueron los empresarios y las empresas que tuvieron que pagar más de setecientos millónes de euros no previstos

comparto con quien también lo ha manifestado que estamos ante una iniciativa que tiene bastante de reiteración y quizás de eventos

convendría que pudiesemos contribuir a aclarar

de confusión qué es lo que tiene que tratar esta cámara qué es

esta cámara también a tenor de algunas intervenciones

no solamente de la propuesta inicial y de las enmiendas presentadas

que este es un asunto todavía vivo en la medida en que está reciente el pago de la multa en la medida en que

de euros que son demasiados junto con todos esos gastos que han significado no solamente algunas defensas de lujo sino también algunas grandes comitivas y viajes a bruselas a saber qué hacían

en fin sumado todo eso estaremos hablando de bastante más de treinta millónes de euros y parece que como ya el veintinueve de mayo tuve la oportunidad de decir

plantear que esto es un gran escándalo es algo que salta a la vista que tampoco uno necesita ser un lince para decirlo

un gran escándalo estamos ante una utilización indebida y fraudulenta

político de recursos públicos estamos en las consecuencias de un acto de chulería y de prepotencia del partido nacionalista vasco y de algunos responsables institucionales del partido nacionalista vasco que en algún caso han estado acompañados por algún responsable institucional del partido

estamos ante un desafío a las sentencias de la unión europea estamos ante una idea nacionalista de que

ensoñaciones están por encima del derecho y universales en todo el universo más allá del ámbito en el que se pueden plantear sus competencias políticas efectivamente estamos ante un cúmulo de despropósitos de hechos graves

absolutamente inadecuados y además estamos como le hemos escuchado a la señora gorospe ante no sé si su convicción o su teatralización

todo desde el primer momento lo que hicieron desde el primer momento hasta

esto solivianta y algunos pueden pensar que se reiteran debates

actitudes contrarias a cualquier actuación razonable en política actitudes de prepotencia y de chulería como aquella del señor bilbao diputado general de bizkaia cuando a la unión europea

la identificación de las empresas que se habían beneficiado de las vacaciones fiscales

este tipo de cosas han sucedido y este tipo de cosas han ido sumando y acumulando

judicial para darle a esta comunidad autónoma al país vasco para endosarle una multa de treinta millónes de euros y esto

es cierto que la señora gorospe y el partido nacionalista vasco quieren tapar todo esto rápidamente con el pago de la multa pero no se puede tapar con el pago de la multa

sus decisiones políticas no son intrascendentes para los ciudadanos la ciudadanía de este país es la que

paga esa multa esa multa nacida de una negligencia tremenda y nacida de una prepotencia tremenda y efectivamente por eso aunque pueda ser reiterativo

porque todavía nadie ha pedido disculpas porque nadie ha asumido el error por eso estamos en un tiempo en el que esto está

aunque tenga elementos de reiteración y de confusión puede ser tratado en esta cámara

como ya se ha dicho una reiteración con lo del veintinueve de mayo plantea que se asuman responsabilidades a eso ya le ha contestado el partido nacionalista vasco no está dispuesto ningún tipo de responsabilidad y plantea además que esto se lleve a la fiscalía bien en relación a la asunción de responsabilidades yo le diría que a partir de aquí solo queda una opción que es darle una vuelta de tuerca a la llave esa vuelta de tuerca quien sepa cómo darla la tendrá que plantear

en esta cámara por segunda vez en el segundo debate que no tiene que pedir disculpas de nada que no se retracta de nada de lo hecho está bien por lo tanto no va a pedir disculpas luego si la política quiere seguir tratando este asunto tendrá que saber el procedimiento o la forma para que quien

inducidamente pueda asumir esas responsabilidades pero yo creo que esto también está ya en un cierto colapso y por lo tanto en fin que este asunto de forma retórica no lo volvamos a tratar sino que en todo caso si hay que tomar alguna decisión sea de verdad una decisión sea una acción política y no otra cosa en segundo lugar en relación con su iniciativa

un sindicato que presentó ante la fiscalía sus planteamientos y la fiscalía ya ha hecho una apertura de diligencias y por lo tanto este es un tema en el que ya está

y habrá que seguir el curso con independencia de lo que en este aspecto pueda hacer el parlamento en el día de hoy ya está en la fiscalía y además curiosamente no sé

pero está hecha esta iniciativa en las fechas que aproximadamente

presentó ante la fiscalía también su correspondiente denuncia

es un asunto que ya está en marcha es un asunto que efectivamente es grave

es un asunto sobre el que si los responsables no quieren poner luz habrá que buscar elementos de ayuda y de apoyo

pero antes de hacer un pronunciamiento sobre eso quiero terminar con dos cosas la primera

al señor maneiro sirve para toda la cámara pero le quiero

porque probablemente puede ser uno de los más proclives a hacer este tipo de cosas la señora gorospe decía que hoy en esta cámara se judicializa

cuando no se tiene otra cosa que decir pero efectivamente hoy en esta cámara se pretende hacer un pronunciamiento sobre ir a la fiscalía

decir a toda la cámara como grupo parlamentario que no estaremos detrás de iniciativas

planteen esto en lo sucesivo de ninguna de las maneras porque a la fiscalía puede acudir un ciudadano puede acudir un grupo político puede acudir quien quiera y además a la fiscalía hay que acudir cuando se tienen indicios y pruebas de delito porque sino uno es cómplice de lo que está pasando

aquellos quienes sean que tengan y que crean que con los indicios y las pruebas pueden ir a la fiscalía

entre que se anuncia esto y se sustancia esto o se termina yendo a la fiscalía si es que se va es un tiempo en el que se pueden destruir pruebas en el que se pueden hacer desaparecer cosas

por tanto con la justicia no se juega a la justicia se va

a la justicia se acude y se acude poniendo en manos del fiscal o poniendo en manos de los tribunales

y que por lo tanto con sus medios y con sus facultades tienen la obligación de verlos por lo tanto espero que para el futuro

como yo personalmente lo he hecho en una ocasión cuando alguien tenga algún indicio vaya colabore y haga lo que tiene que hacer le quiero plantear antes de hacer un posicionamiento definitivo que lo haré en el turno de réplica le quiero preguntar al señor maneiro porque me ha parecido que su presentación de iniciativa ha sido un tanto descafeinada un pelín light le quiero preguntar

de los responsables forales hay tres diputaciones hay tres diputados generales en esa época hay tres diputados de hacienda hay que plantear a quién se le quiere pedir la responsabilidad porque a fecha de hoy parecería que pueden ser a los actuales

pedir responsabilidades políticas y que den la cara y que respondan hay que decir a quién se le pide eso no se le puede pedir a un universo

en segundo lugar aunque sea ya un poco innecesario porque ya está en

fiscalía este asunto yo le quisiera plantear si usted quiere

parlamento promueva una acción que tiene un recorrido judicial qué indicios qué pruebas qué planteamientos concretos nos puede usted ilustrar para hacerse ganador de nuestros votos

presidenta me está costando conseguir los votos de los parlamentarios para sacar adelante esta iniciativa que yo pensaba que no era tan complicada de entender pensaba que era bastante razonable

en aquel día veintinueve de mayo y teniendo en cuenta que es lo que ha pasado desde entonces desde la reunión del consejo vasco de finanzas y el silencio

en relación a las responsabilidades políticas que les corresponden pensaba que no iba a ser tan difícil lograr el voto no solo del señor txarli prieto sino del resto de los diputados

tampoco pasa nada porque tal como decía el señor prieto pueden presentarse más o menos nuevas iniciativas que incidan en esta cuestión porque ya digo que no vamos a dejar pasar este asunto

que los ciudadanos tengamos que pagar treinta millónes de euros y no se señale con nombres y apellidos quiénes son los responsables políticos de esa situación evidentemente representantes fundamentalmente del partido nacionalista vasco

quedó clara la posición de los distintos partidos políticos en aquel debate y es cierto y se aprobó además una enmienda nuestra lo que pasa que ya digo que han pasado cosas sobre todo no ha pasado algo importante y es que

desde entonces lo máximo que hemos visto ha sido un espectáculo lamentable en el consejo vasco de finanzas donde unas instituciones se atacan a otras y olvidando lo fundamental y lo fundamental es que son los ciudadanos los que van a pagar

ya digo que nadie ha dicho nada en todo este tiempo nadie ha asumido su responsabilidad y nadie ha pedido perdón y nosotros no estamos dispuestos a que este asunto quede así y por eso hemos traído este asunto a este parlamento nuevamente

parece usted del partido nacionalista vasco con esa actitud insultante y chulesca negativa a asumir su responsabilidad parece que aquí nadie puede criticar nada de lo que haga el partido nacionalista vasco parece que el partido nacionalista vasco todo lo hace bien y nadie puede osar a criticar sus actuaciones que ya van siendo unas cuantas en los últimos meses en los últimos años

han protagonizado perjudicando gravemente los intereses de los ciudadanos vascos

de los asuntos públicos o políticos ya pero es que las responsabilidades políticas tampoco las aceptan lo hemos visto recientemente en el dictamen de la comisión de investigación de epsilon e hiriko es decir no aceptan la judicialización de los asuntos públicos que pueden ser

las responsabilidades políticas de sus propios dirigentes parece ser que lo que el partido nacionalista vasco propone y defiende es sobre todo defender al partido nacionalista vasco

tuviera la culpa de las cosas que están pasando en euskadi en los últimos tiempos esa es su obsesión la obsesión del partido nacionalista vasco defender al partido nacionalista vasco en ibarzaharra defender las corruptelas de determinados cargos políticos del partido nacionalista vasco

en el caso epsilon e hiriko defender las ayudas ilegales a determinados medios afines al partido nacionalista vasco y tantos otros casos abiertos ese es su objetivo fundamental a los cargos políticos del partido nacionalista vasco y defender al partido por encima de todo no son ustedes capaces de asumir ninguna responsabilidad

usted dice que vengo aquí a ensuciar la política a desprestigiarla no lo que queremos es limpieza y transparencia y que los responsables políticos de determinadas actuaciones paguen esas determinadas actuaciones y asuman públicamente sus responsabilidades y esto es yo creo que lo fundamental de esta iniciativa el famoso punto tres

instar a los representantes políticos a que asuman públicamente su responsabilidad política y admitan que actuaron de modo injustificables quiénes son

no cumplir el mandato del tribunal de justicia de la unión europea estos son los responsables

pero se niegan a asumir sus responsabilidades efectivamente señor prieto el asunto está ya en la fiscalía lo cual creo que nos da la razón en relación a la necesidad de que este parlamento insta a llevar este asunto a la fiscalía porque motivos haylos y ha quedado de manifiesto usted decía

que alguien tiene que responder por ello y no se puede tapar este escándalo con el pago de la multa esa es la cuestión y usted lo ha resumido perfectamente bien

ustedes que votar a favor de nuestra iniciativa porque alguien tiene que responder por esto esto no puede quedar así son treinta millónes de euros no es un error libérrima de determinados representantes políticos que gobernaban las diputaciones forales desde el año dos mil seis que se negaron a cumplir el mandato del tribunal
de justicia de la unión europea maneiro jauna amaitzen joan y nosotros no queremos que esto
así y vamos a intentar que esto no quede así y si esta iniciativa no se aprueba hay otras opciones pero queremos que los responsables políticos asuman su responsabilidad aunque sean del partido nacionalista vasco no hay que tener miedo

en fin yo creo que la iniciativa razonable entendible todo el mundo la entiende perfectamente bien y por lo tanto por eso pido

berriz esango dugu difama que algo queda

eta benetan que me diga usted qué es lo que tengo que votar con quién tengo que pactar y cómo tengo que hacer política señora gorospe yo sé a quién tengo que votar con quién tengo que pactar y cómo tengo que hacer política

defienda su postura que todavía lo único que hemos visto es decir no hicimos nada todo lo hicimos bien esa es la única defensa que ha trasladado usted a este atril en mayo y en octubre esa es la única defensa eso sí atacar a los demás

con argumentación y no me venga con que la situación era mala con que estábamos así o estamos allá pero si no estamos hablando de eso estamos hablando de la dilación

y otra vez vuelta a lo mismo yo no voy a entrar otra vez a debatir lo que ya debatimos en mayo porque ya lo debatimos y señor maneiro asunto cerrado en falso

se hablaba de responsabilidades lástima no consideraron oportuno que esas responsabilidades fuera la que saliera

que no volverá a ocurrir podemos estar de acuerdo pero señor maneiro usted ha puesto esta propuesta encima de la mesa hemos hecho una enmienda usted sigue teniendo no a bien no hablar con esta servidora y como comprenderá señor maneiro

porque si quiere sacar sus propuestas hacía delante con su voto únicamente no le sirve eskerrik asko pinedo andrea

a repasar quiénes estuvieron la composición de las diputaciones forales porque ya lo hicimos en mayo pero le recuerdo que la legislatura del noventa y nueve al dos mil tres gobierno del pp del dos mil tres al dos mil siete gobierno del pp en álava por tanto si estamos hablando de la recuperación y de responsabilidades aquí no se puede hablar continuamente solo del partido nacionalista vasco sino que como hemos dicho antes las responsabilidades serían compartidas entre todos

que han estado gobernando las instituciones vascas como decía antes eusko alkartasuna también o el partido popular también el partido nacionalista vasco también y el partido socialista también que fue quien gobernaba en gobierno de coalición con el partido nacionalista vasco

hacer ese acuerdo institucional para reactivar la economía

y adoptar medidas para generar empleo en una situación que sí pinedo hay que recordar tremendamente crítica

de paro juvenil cómo no vamos a hablar de la situación que entonces se estaba viviendo diez puntos de desempleo por encima del que actualmente estamos viviendo en una situación absolutamente crítica señor prieto el pnv actuó según consideraba que debía actuar

en su interpretación de la legalidad por eso defendió hasta el último momento todos los pasos que había dado y como he dicho

absolutamente razonable defender lo que uno considera que ha hecho bien

defendiendo y también he dicho que acatamos la sentencia del tribunal de justicia de la unión europea

no se remitió toda la información que se solicitaba y esa información tenía el volumen que tenía con el respeto y la cortesía

interinstitucionales verdaderamente señor maneiro usted cree que si el tribunal de justicia de la unión europea hubiera advertido algún indicio hubiera visto alguna conducta susceptible de ser sancionada penalmente

a que lo hiciera después de tantos años de litigios de abogados de instituciones implicadas y usted cree que tiene que venir upyd

situación verdaderamente consideramos que debemos reflexionar sobre el hecho de desarrollar la labor de oposición por la vía judicial y por la vía que usted emprende de desprestigiar y ensuciar porque como he dicho antes lo que usted pretende

lo que es incapaz de lograr en las urnas porque insisto

y sabe diferenciar conductas y actuaciones y sabe realmente quién ha aportado algo para lograr que mejore la calidad de vida de las personas que viven en euskadi y lo que el partido nacionalista vasco puede presentar

en todo lo que a lo largo de su larga trayectoria ha propuesto realmente

qué ha aportado upyd en positivo a la sociedad vasca eskerrik asko eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta el señor maneiro no sé de qué se extraña de que el pnv le defienda al pnv

creo que entra dentro de lo normal ahora de los tres usted ha presentado cuatro puntos y esta pregunta también se la tengo que hacer también al señor prieto los dos primeros se votaron el cuarto usted dice

entonces la novedad es les exigimos responsabilidades a las diputaciones

esta cámara este parlamento a quién exige responsabilidades a quién tiene capacidad de exigir responsabilidades políticas

a todo el mundo todo el mundo no no sí a todo el mundo al congreso

hombre a mí en este debate que tanto se plantea de las responsabilidades de las diputaciones forales

no voy a repetir el discurso pero parece lógico que si alguien tiene que pedir responsabilidades políticas a representantes forales son las juntas generales de los territorios

y por cierto a día de hoy no he visto a ningún grupo que lo haya planteado en ninguna de las tres y cuando digo ninguno es ninguno

explicar y decir a lo mejor en la primera intervención no se me ha entendido bien es que de los cuatro puntos ninguno vale salvo ojo

entonces aquí sí que podríamos empezar a tener un pequeño problema

y entonces le exigiríamos responsabilidades al gobierno de por qué ha pagado la multa cuando el parlamento ha dicho que no se pague la multa es decir esa es la única novedad la única novedad desde hace cinco meses en esta propuesta que ustedes nos traen y señor prieto

las responsabilidades son por aprobar las normas son por gestionar mal la aprobación de las normas

que no comunicaron a la comisión las vacaciones fiscales

el partido socialista en las tres y el partido nacionalista vasco en las tres o sea que señor prieto no nos hagamos trampas en el solitario

es que en el año noventa y seis el partido popular llegó a la diputación de álava ya y en el año noventa y seis había exigencia de devolución de ayudas no ni siquiera recursos que es posterior

por qué se impugnan quién impugna las vacaciones fiscales

ese fue el inicio por las ayudas a daewood por parte de fagor y desde cuándo hay obligación real de pedir el dinero pues vamos a ver quiénes estaban ahora

si alguien está tan interesado en pedir responsabilidades pídanlas donde toca donde corresponde en las cámaras que son las competente para ello no perdón

pídanos la responsabilidad de los ministros de los comisarios europeos

pues aquí vamos a pedir responsabilidades a quien al señor maneiro se le ocurra en cada momento o al alcalde del pueblo que se le ocurra al señor maneiro en cada momento

en fin algunos todavía a este parlamento lo respetamos un poco pese a que haya otros que parecen empeñados desde hace tiempo en

un altavoz de no sé qué exactamente qué cosas y por cierto si usted tiene conocimiento de un delito a usted se lo han dicho ya pero

usted puede estar cometiendo un delito y a lo mejor lo que hay que plantearse es a ver si vamos a tener que ir los demás a la fiscalía porque usted lleva

y nosotros ya empezamos a ser conscientes de que igual usted ha cometido un delito los de bildu que están

satisfecha con lo que se ha hecho en este asunto me gustaría preguntarle si considera que esto es un éxito de su partido y de la gestión de su partido

si usted está satisfecha de que haya que pagar treinta millónes de multa más los gastos

judiciales más los gastos de defensa más los gastos de comitivas no sé si esto le produce satisfacción no sé si hoy está

defendiendo esto en nombre de su partido no cree más bien que esto es un escándalo porque

que en el año dos mil seis una sentencia ustedes le dieron una patada dijeron que no la cumplían porque no les daba la gana y eso finalmente

han ejecutado la sentencia y les han metido una multa y eso está sujeto al estado de derecho

darle una patada a las sentencias eso es ajustarse al estado de derecho incumplir las sentencias es ajustarse al derecho y es defender el derecho esto es lo que ustedes han hecho y yo creo que esto es lo suficientemente vergonzante

y además dañino para la política para lo público para los recursos de todos los ciudadanos que cuando menos tendría que haber salido aquí con un tono de cierta humildad

en nombre de su partido o de los responsables institucionales de su partido que fueron los promotores de este desaguisado pero en fin esto no está dentro de la parte

de su partido y por lo tanto ustedes cuando cometen el error cuando lo hacen mal cuando dañan la política y dañan a los ciudadanos además exhiben su prepotencia y vuelven a reiterarse en que todo lo hecho ha estado estupendamente hecho y por eso nos vemos en la obligación de tener que abordar de nuevo aquí esto y quizás lo tengamos que abordar más veces por esta actitud política tan nefasta señor maneiro usted tendría que haber ido a la fiscalía el veinticuatro de julio exactamente

registró esta iniciativa aquí usted se supone que tenía indicios y pruebas suficientes para intuir un delito y para proponérselo a la fiscalía para que hiciera la investigación entonces tendría que haber ido

efectivamente como desgraciadamente vamos a ver al final

probablemente usted no está tanto en el efecto político que parece buscar a través de esta iniciativa

y una cierta publicidad esto lo vamos a ver enseguida dos minutos faltan en las votaciones

si loque une a los parlamentarios y parlamentarias de esta cámara es un objetivo político que se considere

o interesante para un momento como el actual porque vamos a ver si las votaciones finales se producen por objetivos políticos o se producen

con interferencias de animadversiones políticas o de animadversiones personales

si fuera así esto también sería parte del escándalo nosotros vamos a actuar con la coherencia del veintinueve de mayo

una posición favorable a los dos primeros puntos que se reiteran luego obviamente votaremos a favor a continuación nosotros ya pedíamos responsabilidades políticas

votaremos a favor y además plantea que hay que ir a la fiscalía aunque ya han hecho una serie de advertencias recomendaciones o como usted quiera llamarlo pero en cualquier caso fíjese de que esta cámara dijera de no ir a la fiscalía cuando la fiscalía ya está actuando

diga que hay que ir a la fiscalía votaremos también a favor de esto pero si no sale lo suyo también pediremos una votación por puntos

en la misma línea de bildu y también podrían salir adelante podría salir su iniciativa porque según los discursos políticos en esta cámara si son serios y de verdad la suya tendría que confitar una mayoría de votos y si son serios y de verdad la suya

una mayoría de votos si es así lo veremos si no es así será una trampa política

porque esta cámara si alguien piensa que es un escenario de pitorreo de propaganda

uno y dos y tres bozkatuko dugu lehenengo puntua bozkatu dezakegu